gracias señora presidenta señores consejeros señorías buenos días señora consejera durante los últimos

como le decía planes renove para distintos sectores de la actividad económica ventanas electrodomésticos muebles calderas maquinaria

además se han firmado acuerdos entre entidades financieras y gobierno vasco para impulsar la financiación del crédito comercial ayudas para autónomos pymes y emprendedores en junio de dos mil once y en mayo de dos mil doce el consejo de gobierno aprobó convenios de

aproximadamente diez meses se firmó también un acuerdo con entidades financieras para movilizar seiscientos sesenta y seis millónes de euros para el sostenimiento de la actividad productiva

esto ha sido bueno para la reactivación económica está siendo bueno para el mantenimiento de determinados puestos de trabajo y nosotros reconocemos que es una labor importante e interesante y que hay que hacerla

que en este momento tienen muchísimas explotaciones agrarias especialmente ganaderas y especialmente explotaciones de leche

la necesidad que tenemos de incorporación de jóvenes a la actividad agraria la necesidad de relevo generacional y las dificultades de liquidez

por primera vez en la actividad agraria por eso señora consejera le preguntamos

trescientos y su objeto es permitir el acceso a esa financiación bancaria que es difícil en un determinado momento de ciertos colectivos con necesidades de circulante

y demás adecuación en definitiva a las necesidades que se están produciendo en este momento en esos pequeños y medianos empresarios y sobre todo

ese decreto establece que la línea de financiación está abierta en todos los sectores de la actividad económica posteriormente la orden de veinticinco de marzo de dos mil trece

de euros como decía pero de ese importe doscientos ochenta millónes de esos trescientos iniciales doscientos ochenta millónes de euros están destinados a pymes y veinte millónes a profesionales autónomos y empresarios individuales en consecuencia consideramos que nuestras vamos a decir nuestros profesionales también de otros sectores como puede ser

está incluido en ese fondo porque lo hemos abierto específicamente a todos los sectores y de momento hasta hacer la evaluación de esos trescientos millónes no consideramos necesario la creación de un fondo específico ahora bien

que es lo qué ocurre cuánto se ha solicitado en cada uno de esos ámbitos y si fuera necesario estableceríamos medidas adicionales eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

yo le puedo decir que he tenido la oportunidad de seguir los pasos de dos solicitudes de financiación

en dos actividades diferenciadas dentro del sector primario

le tengo que decir que después de ser asesorados a qué entidad acudir y cuál era la más adecuada para sus necesidades fueron conducidos a oinarri entidad que trabaja muchísimo con el sector primario pero la farragosa tramitación y la imposibilidad cumplir con las exigencias que les plantearon las operaciones fueron fallidas y a pesar de esto y su interés era tal que han buscado soluciones privadas

aportar hoy son dos jóvenes uno ganadero otro agricultor

desde la administración les hemos puesto muchas pegas y es que el sector primario tiene unas especificidades que cuando es el sector primario

y tienen otros tipos de avales y otras circunstancias y donde realmente se genera problema

un joven que se va a incorporar que realmente no tiene nada para cualquier tipo de explotación ganadera agrícola se necesita inicialmente una cantidad de dinero importante y esa liquidez es la que no tenemos

sistemáticamente que el sector primario es un sector estratégico pero es que a veces no actuamos como tal y eso desespera y eso no favorece cumplamos con ese objetivo que es incorporar jóvenes al sector primario modernizar las explotaciones que sean explotaciones eficaces y eficientes que respondan con todos los parámetros de legalidad y todos los cumplimientos que deben de tener para hacer un tipo de producción acorde con las necesidades del momento yo creo que es

tal como comentaba señora lópez de ocariz este programa de apoyo financiero que posibilita

ha incluido por primera vez específicamente al sector agrario al sector pesquero como sector primario además del agroalimentario

herramientas por mejorar posiblemente luego lo que tal como le comentaba previamente

haremos una evaluación de esos proyectos qué dificultades han tenido porque en ocasiones no son solamente dificultades por administración farragosa como usted decía tienen otras dificultades técnicas

vamos a intentar facilitarlo como también lo hemos hecho en el ámbito del comercio que es parecido es otro sector pero tiene dificultades similares y sin duda
tomo en cuenta su aportación y valoraremos y analizaremos como mejorar esta herramienta muchas gracias eskerrik asko

egun on la crisis sirve para todo no solo justifica los recortes sino que encima oculta los fracasos más absolutos de la gestión pública y de las burbujas que se generan desde la política con proyectos que huelen a todo menos a transparencia recuerdo de epsilon donde ya me referí a que hiriko era otro posible fiasco más de la política

en aquel debate se me recordó desde la bancada del pnv que hiriko era un proyecto que seguía vivo y en el que se mantenían las esperanzas

durante estos tres años aproximadamente ninguno de los modelos coches y furgonetas eléctricos

el mercado no existe por culpa de los intereses relacionados con las energías fósiles pero lo que sí que existe es la política mediática que promete puestos de trabajo que luego no existen que promete crecimiento económico que luego no existe que promete mucho a cambio de mucho dinero pero como siempre quien cumple es el sector público y nunca el privado

de las famosas electrolineras ibil las cuales puso en marcha el gobierno vasco a través del eve junto a repsol en qué situación se encuentra ese acuerdo nos encontramos más cerca de las doscientos cincuenta electrolineras con las que empezaría el programa o de las siete mil o trece mil que se esperaban en unos años cuánto han gastado las arcas públicas en ese proyecto

por el que la empresa se comprometía a invertir en las plantas de euskadi para fabricar componentes para automóviles eléctricos

aunque no es raro del todo cuando el ex director de mercedes pasó a dirigir el proyecto hiriko

y una apuesta de futuro y que salvo que usted quiera hablarme de lugares donde cargar baterías de móviles no estará diciendo la verdad

y no de financiación ya la única manera de que el automóvil eléctrico triunfe y pueda tener cierta viabilidad es actuando de manera valiente contra las empresas de energías fósiles

como por ejemplo repsol tanto ustedes como el pse creen que pueden pactar con el diablo y vencerle aunque para ello tengan que vender su alma como lo están haciendo con el fracking

garapen teknologikoa izatea hori ahaztu gabe se trata por tanto de una idea novedosa

a una investigación muy importante que nace de un grupo de investigación del instituto tecnológico de massachussets bien reconocido y reconocido mundialmente

como en la ingeniería en general ellos han trabajado en el desarrollo de esta idea de la mano

hasta el año dos mil ocho y en dos mil ocho empiezan una colaboración con euskadi fruto de la cual la propiedad intelectual de un primer prototipo de investigación desarrollado con un laboratorio denominado media leab allí

aparece en euskadi en dos mil diez es un proyecto de investigación muy novedoso por tanto lo que decía

este proyecto inicialmente por tanto está ligado más a esos fondos de investigación de los que ha tenido tanto recursos del ministerio de ciencia tecnología e innovación alrededor de quince millónes de euros etorgai del gobierno vasco alrededor de dos setecientos y otros por un importe alrededor de sesenta mil euros en total

en investigación y el desarrollo del producto hasta el momento de la investigación ha sido un éxito ahora toca pasar de la investigación al prototipo y a la puesta en marcha

y el desarrollo que se ha obtenido también es muy importante y muy exportable en este momento beraz

que concedieron en un medio de comunicación ellos mismos decían que era un proyecto que sí que a nivel de investigación avanzaba y generaba nuevas oportunidades pero que si no se estaba poniendo en marcha en estados unidos y si ninguna empresa lo había cogido

tres años se nos vendió que un proyecto que iba a generar empleo

unas nuevas oportunidades no solo la investigación sino la puesta en marcha y que para el dos mil catorce si no me equivoco dos mil trece finales

parado la fabrica no funciona hace dos semanas que los trabajadores

a trabajar y eso es por lo que se le preguntaba en qué momento está ya sé que la investigación se hizo el problema es y ahora qué qué va a pasar con este proyecto

y que exigió mucho dinero público y que ahora siguen reclamando los inversores privados

vuelva a manar dentro del proyecto porque sino no tiene ninguna viabilidad

que es la que en este momento hay que poner en marcha y a partir de ahí el gobierno vasco una vez homologado tiene plena voluntad de continuar trabajando como en otros proyectos con fondos de capital riesgo pero el proceso de homologación entendemos que es absolutamente privado
y es el momento en el que está eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea denbora agortu zaizu

andrea la comunidad autónoma del país vasco tiene competencia plena y exclusiva en materia de vivienda

pero en relación al ejercicio de dicha competencia en materia de vivienda cuando afecta a la política de inmigración debe tener en cuenta lo estipulado en la ley orgánica cuatro barra dos mil

la ley orgánica cuatro barra dos mil ha experimentado diversas modificaciones

y en la redacción actual siguen fuera los empadronados sin permiso de residencia y quedan fuera también aquellos que no tienen un permiso de residencia de larga duración

de esta manera lo que hace es cumplir de alguna manera con lo estipulado en dicha ley orgánica no obstante la función del gobierno

va más allá de lo estipulado en dicha ley orgánica puesto que puede ser compatible en este caso

pero sí poder acceder a una vivienda en arrendamiento eskerrik asko aburto jauna

baten bidez bizitzeko baimena edo txartela aurkeztea documento que evidentemente no pueden presentar y además de esta manera se les obliga a realizar un trámite

no quisiera pasar por alto una cuestión realmente importante el principio de ciudadanía inclusiva un principio que si bien se recogía en el primer plan de inmigración en el plan vigente no se menciona

y además de las consecuencias injustas que esto supone el incumplimiento de este principio acaba con un consenso previo en esta materia

utzi ditu por tanto es un colectivo vulnerable muchas veces en riesgo de exclusión social por su propia condición que aspira a vivir en euskadi con dignidad solo eso y llama poderosamente la atención que por una parte el ayuntamiento de bilbao anuncia la apertura de un servicio municipal

para paliar las injusticias que están dejando a cientos de familias en la calle

tenemos el convencimiento de que la orden del quince de octubre de dos mil doce supone un paso atrás otro paso atrás en el reconocimiento de los derechos de estas personas inmigrantes un paso atrás que el gobierno está a tiempo de enmendar por eso

que a día de hoy se están vulnerando debería recapacitar y posicionarse en contra de la orden aprobada por el gobierno anterior y derogarla beraz zain gaude eta

bai mahaiburu andrea en este apartado cumplimos la ley no dejamos desamparada a las personas inmigrantes demandantes de vivienda y de verdad le digo que no creo que este consejero en su trayectoria sea sospechoso de esa cuestión

en euskadi vamos más allá de lo que permite la ley orgánica cuatro barra dos mil la ley de garantía de ingresos

sin exigir ninguna autorización de residencia el sistema vasco

que garantiza esa sociedad inclusiva a la que usted hacía referencia el hecho de que las personas extranjeras en situación irregular no puedan acceder al registro de solicitantes de vivienda

bien por no cumplir el requisito de residencia u otros de los requisitos en etxebide no debe ser óbice para que esa persona pueda acceder a una vivienda en arrendamiento por eso el gobierno mantiene la prestación complementaria de vivienda sin ningún tipo de requisito de quince de octubre de dos mil doce del anterior consejero de vivienda obras públicas y transportes se mantiene en vigor es verdad que la estamos analizando porque puede ser necesaria

entendemos que el derecho a la vivienda no es un derecho a la propiedad de vivienda por lo tanto entendemos

papeles en regla y pudieran ser expulsados por otra administración parece lógico que no debieran acceder a una vivienda en propiedad cuestión bien diferente es lo que hace respecto al alquiler de vivienda es por eso que mantenemos la prestación complementaria de vivienda analizaremos la orden

en todo caso le voy a trasladar no una reflexión sino una realidad porque a veces

reglamento de donostia etxegintza seguro que conocen ustedes bien requisitos para la inscripción en el registro municipal de solicitantes de vivienda

contar con trabajo en donostia san sebastián la residencia deberá constar en el padrón municipal y el trabajo acreditarse mediante certificado

compare esto con lo nuestro y luego seguimos hablando eskerrik asko

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta buenos días
señoras y señores parlamentarios señores miembros del gobierno y especial señora

bien esta es una interpelación en la que queremos proyectar desde el parlamento el mejor esfuerzo para que el museo guggenheim bilbao salga reforzado para los próximos años para los próximos veinticinco años o los que tengan que ser veinticinco como mínimo después de las negociaciones que se deberán efectuar en relación con la renovación del convenio y de los acuerdos con fecha dieciocho de junio de dos mil doce

debatió y aprobó en su seno una resolución en relación con el informe de la ponencia de análisis y de evaluación de la trayectoria del museo guggenheim bilbao en esa ponencia a través de una proposición no de ley aprobada el veintiuno de diciembre de dos mil nueve participaron

parlamentarios en ella a través de dieciséis sesiones de trabajo participaron veintiséis personalidades

de la universidad la política los medios de comunicación vinculadas de una u otra manera con la experiencia guggenheim

en el país vasco desde el ámbito de la universidad o desde el ámbito de la cultura de la creación artística etcétera

en ese informe una serie de consideraciones aprobó diecinueve recomendaciones con el fin de que en la renovación del acuerdo entre el museo guggenheim bilbao

se viera reforzada de cara a establecer una posición paritaria

graves errores algunos déficit que se han podido detectar lógicamente

algunos en la gestión pues bueno o algunos en su función de centro de arte

exitosa pero también inicial primaria

algunas cuestiones parece ser y la reflexión nos lleva a decir que son

que es necesario profundizar en su mejora y que en el marco del convenio y del acuerdo del año que viene pues será un escenario

el informe de la ponencia es claro es completo interesa a este grupo parlamentario

la opinión del nuevo gabinete nuevo gabinete ya con unos cuantos meses esta interpelación fue de febrero pero tiene

las aportaciones históricas de fondos que se materialicen los presupuestos generales de la comunidad autónoma vasca y de otras instituciones públicas el guggenheim

nos preocupamos por ello señora consejera estamos en un momento además oportuno para hablar de estas cuestiones dos mil catorce es la fecha de firma de otro acuerdo de ese acuerdo entre la parte vasca y la americana

sin duda alguna la moción que debatamos es donde queremos trabajar es cierto que en una pregunta parlamentaria usted contestaba al señor reyes puntualmente sobre un par de cuestiones relacionadas con el dictamen y hacía dos referencias que para nosotros nos resultan de interés

en un proceso más amplio de evaluación de los objetivos y resultados alcanzados en el periodo de

catorce y otra cuestión crea un proceso de análisis de la trayectoria los objetivos y resultados del periodo de vigencia del acuerdo

que ahí están nosotros entendemos que ese proceso de análisis y evolución ya estará en marcha

juntamente con otras instituciones juntamente con la parte vasca y el proceso de negociación de alguna manera seguro que también ya que en dos mil catorce hay que cerrar ese nuevo acuerdo y yo creo que esas cuestiones se preparan con tiempo que es lo que quisimos hacer también en el análisis en la ponencia parlamentaria que con un tiempo

anticipándonos quisimos hacer ese análisis y esa evaluación y hacerlo sobre ese análisis que tendrán que hacer ustedes y esas negociaciones sobre bases nuevas

una mejor posición del museo guggenheim bilbao por lo tanto

de la parte vasca en la siguiente andadura artística de la pinacoteca

y sobre todo las recomendaciones que buscan dar más potencia a la parte vasca en la futura negociación con los americanos se realizaron una serie de consideraciones

pero la necesaria ampliación de la evaluación y su impacto a otro sectores todavía inexplorados yo creo que

terreno en el que andar sobre todo terreno a pie de lo local a pie de nuestro arte de nuestras

en el informe también sobre el contexto y la naturaleza del acuerdo firmado en mil novecientos noventa y uno y los tiempos que han cambiado también

o sea ese acuerdo entre el gobierno vasco diputación foral de bizkaia y solomon r guggenheim foundation lógicamente el contexto también

también esas consideraciones se referían a la necesidad de adecuar el acuerdo a ese nuevo contexto

no es un voluntarismo no es un deseo gratuito yo creo que hay

en el núcleo estratégico de la red guggenheim de una manera más efectiva la decisión etcétera y sobre el avance

y de los procedimientos de adquisición de la colección han sido cuestiones

donde siempre se ve la posibilidad de mejorar también sobre la necesidad de profundizar en la relación

con el arte vasco con la universidad vasca con la creación vasca eso es se ha detectado como posibilidad de mejora y ahí está

a tener en cuenta sobre la creación de una dirección artística

de la de gestión sobre la composición del patronato consideraciones sobre la dimensión didáctica del museo sobre la formación de recursos humanos sobre la necesidad de enmarcar al museo guggenheim bilbao en el contexto de políticas culturales de la administración vasca

sostenido con dinero público todavía tiene posibilidad de implicarse más en la política cultural vasca con mayúsculas

que es un elemento importante que se detectó y que los expertos y las personas que vinieron

nos las pusieron de manifiesto y también sobre una posición fuerte

sobre algún incumplimiento por parte de la parte americana de algún punto del acuerdo de mil novecientos noventa y uno sobre todo en relación con la rotación de fondos el reforzamiento de la colección de arte vasco y español que se decía en relación con que el museo guggenheim el museo americano tenía que ser más activo en esa adquisición y en esa vinculación al museo vasco y español y

que ahí están vuelvo a decir estamos en un momento

la parte vasca tiene que hacer su reflexión sus planteamientos

son interesantes puntos de actuación pautas de actuación sin duda ineludibles a la hora de hacer ese análisis definitivo en relación con lo que tiene que ser la negociación para mejor para que la parte vasca

y en ese sentido nosotros presentamos la interpelación a la consejera de educación política lingüística y cultura

los propósitos del gobierno vasco en su posición patronal dentro del museo guggenheim bilbao en relación con la

guggenheim a la vista del informe realizado por la ponencia de análisis y evaluación de la trayectoria

interpelación señora consejera constructiva nosotros queremos trabajar con ustedes en reforzar

a la fundación vasca a la posición de las instituciones vascas de la que usted representa de la diputación foral de álava y en definitiva dar más potencia

la creación de una ponencia en el seno del parlamento vasco con el fin de realizar un profundo análisis al objeto de alcanzar los mejores acuerdos de renovación posible para todas las partes y especialmente para la vida y el bienestar de la ciudadanía vasca

ante todo que la renovación de ese acuerdo suscita el interés y la atención de nuestra sociedad con esa misma atención abordamos nosotros el proceso de negociación

la renovación del acuerdo vigente debe materializarse a finales del año dos mil catorce para ello el gobierno vasco

elaborarán una reflexión conjunta y establecerán una estrategia común hasta el momento se ha venido trabajando en un análisis propio de la situación por parte de cada institución ahora damos un paso en la fase de puesta en común

y la diputación que comenzarán a celebrarse en el mes de junio estableceremos un método y un cronograma y un primer corpus de documentos

entre ellos el emitido por esta cámara tiene un lugar preeminente por supuesto llega el momento de concretar las recomendaciones y consideraciones de este parlamento

para lo cual es necesario conocer la posición de los interlocutores recavaremos la colaboración del director del museo guggenheim de bilbao

guggenheim y realizaremos las consultas técnicas que se consideren necesarias a continuación pasaremos a la fase de definición de la estrategia

y prepararemos la renovación del acuerdo nuestro objetivo común es claro

un futuro de mayor dinamismo y de mayor impacto cultural social y económico estamos trabajando en ello y continuaremos trabajando en esta línea de manera coordinada y en un clima de máxima colaboración con la diputación foral de bizkaia

el calendario de trabajo fijado tiene una fecha clave ya se ha dicho diciembre de dos mil catorce

tiempo suficiente para definir la posición de las instituciones vascas defenderlas y negociarlas ante nuestros socios en nueva york y también tiempo de plantearlas ante la sociedad vasca
a través de este parlamento eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea

muchas gracias presidenta quiero agradecer a la señora consejera su intervención en relación con la respuesta a esta interpelación efectivamente yo creo que es el camino ella misma lo ha dicho usted misma lo ha dicho el gobierno vasco intervenir

actuaciones que se mueven con dinero público la ciudadanía lo exige efectivamente más en tiempos

que agradecer porque en algún momento se dudó de ello el trabajo interesante que usted ha reconocido del dictamen de la ponencia parlamentaria que lo fue efectivamente objetivamente

y que en ese sentido parece que el gobierno lo reconoce y que va a formar parte de ese núcleo de ese conjunto de cuestiones que conformarán la voluntad de la parte vasca que es lo importante ahora

en conformar esa voluntad para mejorar el museo porque

se han detectado que son posibles de mejorar y que nunca mejor hacerlo que en esa negociación yo sí que le pediría

ha dicho le iba hacer una pregunta sobre en qué fase están ahora en sus acuerdos

esa comunicación estrecha intensa de posición vasca

que ustedes hayan detectado pero que sea por favor una posición clara

transparente muchas veces las decisiones o alguna vida

de gestión o de decisión en lo que es el interior del museo

de falta de transparencia yo creo que aparte de encontrar una fase de reforzamiento del museo guggenheim bilbao como referencia hay que ser y avanzar en transparencia en

y en que todos sepamos muy bien lo que pasa en los procesos de decisión de esa importante estructura artística yo creo que

en que el esfuerzo que se haga por mejorar en los acuerdos alcanzados por mejorar la posición en relación con la parte americana de la parte vasca

al arte vasco a la universidad vasca como elemento fundamental para convertir al museo guggenheim bilbao y a su importante función como pinacoteca en un verdadera centro

con la fuerza que ha representado y que puede seguir representando las recomendaciones

de la ponencia pero las recomendaciones están ahí

de mil novecientos noventa y uno que permita un contrato más equilibrado esa es la palabra conseguir en el futuro un contrato más equilibrado ahora

la posición preeminente era la americana hoy tenemos que trabajar

que defina al museo guggenheim bilbao como un nodo de primer orden dentro de la red guggenheim

que el museo guggenheim bilbao establezca alianzas estratégicas alianzas artísticas con otras instituciones en el escenario

avanzar que el museo guggenheim bilbao preste más atención a lo que es la

el aspecto económico la atracción turística es muy importante pero ahí tenemos que seguir profundizando por ahí pero en positivo como criterio objetivo

global a experiencias artísticas innovadoras es decir yo creo que estamos que haya un mayor compromiso con la

que sirva de puente eso ha salido muchas veces en los trabajos de la ponencia

y su posición sirva de puente para nuestros creadores para nuestras tendencias que siempre han sido no hay más que ver la creación artística

que estamos todavía y somos referencia en europa y en el mundo de creación artística pues que eso sea sí en ese sentido yo me alegro vuelvo a decir y finalizo

y oportuna la ponencia sus trabajos y que vayan a formar parte del núcleo de decisión en la futura negociación muchas gracias

como estaba diciendo elaboraremos una posición común porque creemos que las instituciones vascas deben actuar conjuntamente en esta negociación buscaremos también el acuerdo con los patronos privados del museo y como hemos citado tendremos en consideración las recomendaciones y las aportaciones de la ponencia ya les he dicho que las reuniones conjuntas empezarán en junio

ninguna posición al respecto por parte de este gobierno en cualquier caso será una posición consensuada

que tendremos bien a compartir cuando llegue el momento preciso con este parlamento eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea

sí gracias presidenta buenos días señora consejera ya tratamos este asunto recientemente en la comisión ya pudimos escucharla

sobre la misma cuestión la asociación de escritores de euskadi en la que se congregan algunos de los autores más importantes de euskadi

y residan en el país vasco o residan fuera del país vasco perderá este año la subvención de su departamento el departamento en cambio mantiene la financiación de sesenta y seis mil euros a la plataforma de escritores en lengua vasca

y las razones de esta decisión política deben ser explicadas en sede parlamentaria parece obvio que unas asociaciones suben y otras bajan por determinadas decisiones de este gobierno nacionalista es decir a unas asociaciones

ven incrementados sus recursos públicos según explica

veinte punto cero euros estamos hablando de veinte mil euros que percibían

fuera de euskadi distintos planes quedarán sin hacerse como la publicación de un libro colectivo sobre la violencia

y a otros se les castiga algo similar ocurre en el sector de los productores vascos la asociación de productores vascos pierde para este año

el año pasado mientras que la otra plataforma del gremio ibaia verá aumentar sus fondos públicos desde los sesenta mil hasta los ochenta mil la asociación de productores vascos nació hace once años y está compuesta por veintiséis productoras y ha desplegado un buen trabajo durante estos años ustedes deciden libremente laminarla también desaparecen las ayudas de veintiocho mil cien

al poeta bilbaíno blas de otero y las ayudas a la histórica sociedad liberal el sitio de bilbao que el año pasado recibió

sorprende el fuerte incremento de los editores en lengua vasca quienes incrementan lo percibido

de este otra vez ocurre lo mismo a unos se les castiga y a otros se les premia

también está la federación de libreros de euskadi en fin por estas cuestiones y sin alargarme más le pregunto señora consejera para que nos explique

por las razones de estas decisiones que nosotros consideramos claramente sectarias gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko sailburuak

me gustaría dejar claro que las decisiones adoptadas con respecto a las diversas líneas de ayuda al sector son una consecuencia clara y directa de un ejercicio de responsabilidad

más adecuada en la actual situación económica un ejercicio de responsabilidad que por otra parte ya anuncié en mi comparecencia de presentación de las líneas estratégicas del departamento

que su máximo interés con respecto a la política cultural de este departamento y de este gobierno

asociaciones que ustedes tienen el empeño de clasificar por la lengua que utilizan sin embargo no parece preocuparles demasiado si dichas subvenciones nominativas

si ese es el camino por el que debemos guiar al sector cultural y si esta es la línea de ayuda que realmente deseamos fomentar

incluso determinados medios de comunicación se nos ha tachado de sectarios por nuestra decisión de reordenar y priorizar las ayudas directas pero acaso no resulta arbitrario ofrecer una subvención nominativa injustificada a un determinado colectivo

creen sinceramente que ante la actual situación económica la única forma que tiene el gobierno de apoyar al sector es la vía de las subvenciones directas

coordinación reorganización y concentración dentro del propio sector no ponemos trabas al asociacionismo por puesto que no

lejos de beneficiar al sector lo perjudica al contribuir a una división de las fuerzas nosotros apostamos por un sector fuerte unido y coordinado dicho esto paso ahora a analizar una a una las subvenciones mencionadas en su pregunta

la asociación de escritores de euskadi al hilo de mi aclaración anterior le diré que la fórmula de las subvenciones nominativas resulta adecuada para aquellas asociaciones o agentes culturales

sin embargo esta fórmula de ayuda no es válida para cualquier situación existen otras posibilidades que pueden resultar más adecuadas en función de la realidad y las circunstancias que lo rodean este es el caso de la asociación de escritores de euskadi que habiendo nacido en el año dos mil diez aun no cuenta con la madurez suficiente para garantizar un trabajo continuado que aglutine al sector de la escritura en euskera o en castellano de modo diferente y que por tanto justifique este tipo de subvención

esto no quiere decir que les neguemos nuestro apoyo o ayuda consideramos que esta asociación

le hemos mostrado todo nuestro apoyo y les hemos ofrecido una línea de colaboración y trabajo común desarrollar un programa basado en proyectos que puedan resultar de interés para el sector esta planificación conjunta podrá garantizar la visibilidad de dicha asociación a lo largo del año así como la estabilidad necesaria proporcionada

de hecho hemos recibido ya una primera propuesta de actividades por su parte y confiamos en que en buena parte del programa pueda optar a la convocatoria de ayudas que ofrecemos

la organización de festivales ciclos concursos certámenes y acciones singulares

en el caso de la asociación de productores vascos le diré que se constituyó en el año dos mil dos

concretamente la asociación de productoras audiovisuales independientes del país vasco

que curiosamente había nacido en mil novecientos noventa y siete como fruto de la integración de las tres asociaciones de empresas audiovisuales existentes en dicho momento desde su creación ibaia lleva a cabo una labor muy interesante de fomento e impulso de la producción audiovisual en euskadi

en este sentido siento contradecirle nuevamente y reitero nuestra postura a favor de la unión y no de la división de fuerzas nos encontramos ante un sector complejo que requiere una clara transformación y una vía de interlocución única con la administración

asimismo cabe mencionar que la asociación de productores vascos carece de una estructura sólida que garantice una labor continuada desde un prisma global sectorial este es el motivo por el cual se les ha invitado a participar en las futuras

con el fin de conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo las actividades previstas para el presente ejercicio el caso de la fundación blas de otero es diferente espero sinceramente que nadie haya pensado que el hecho de retirar esta ayuda puede tener relación alguna

cuyo legado resulta fundamental para este país es más

pero no desde el punto de vista de la promoción cultural sino que lo haremos desde el ámbito de patrimonio cultural que debemos conservar y socializar aprovechando los recursos de los que disponemos para ello trataremos de integrar este objetivo en la universidad en las bibliotecas en los archivos y en los numerosos recursos de que disponemos sin merma de la unidad y el patrimonio de la colección

como puede ver no dejamos de lado la fundación blas de otero sino que le tendemos la mano para caminar juntos hacia una estrategia más efectiva de cara a la conservación y socialización de su gran legado

el sitio cuenta con una enorme tradición de más de ciento treinta años

más que mostrar nuestro máximo respeto por ello sin embargo se trata de un foro de ámbito local cuya actividad no está claramente dirigida a un ámbito sectorial concreto

en cuanto a la asociación española de críticos literarios conviene aclarar que esta asociación solicitó una ayuda para el dos mil once con el objeto de celebrar los premios de crítica en bilbao

sin embargo esta cuantía no se utilizó ni en dos mil once ni tampoco en el dos mil doce porque dicha actividad no llego a desarrollarse en la comunidad autónoma del país vasco es más ni siquiera se ha vuelto a solicitar por su parte por lo que creo que su preocupación no está debidamente justificada en cuanto a las subvenciones para la promoción editorial vuelven ustedes a empeñarse en separar los trabajos desarrollados en base a la lengua oficial en la que se llevan a cabo sin embargo nosotros consideramos que en este ámbito

editan en las dos lenguas oficiales este es el motivo por el cual se ha decidido englobar su actividad en el concepto de producción editorial de carácter literario

aprovecho la ocasión para comunicarle que el departamento de educación política lingüística y cultura ha publicado ya la orden de convocatoria para la concesión de dichas ayudas

también hemos abierto ya el plazo de presentación de candidaturas para optar a los premios literarios de euskadi que premian la calidad de las obras literarias publicadas tanto en castellano como en euskera

traductores e ilustradores en el ámbito de la expresión literaria podemos concluir por tanto que en ningún caso se ha denegado nuestro apoyo a ninguno de los agentes mencionados sino que en un ejercicio de responsabilidad política en busca de un máximo aprovechamiento de los recursos existentes

más adecuadas a las necesidades actuales y a la singularidad de cada caso eskerrik asko

sí muchas gracias señora presidenta gracias señora consejera por sus explicaciones que siguen sin convencernos en nuestra opinión la mayoría de ellas
son excusas ustedes hablan de que

tratan de realizar un ejercicio responsable nosotros pensamos que es un ejercicio evidente

de dirigismo y de arbitrariedad claramente nacionalistas esta es nuestra opinión vistas las primeras decisiones que ustedes han tomado en este asunto

las declaraciones suyas y del viceconsejero en los últimos días algunas de las cuales parece ser y luego se me aclarará espero

formuladas o explicitadas casi como sin querer para luego

cuando fue preguntada por ella por una frase en concreto tratar de rectificar pero son frases emanadas de usted y por lo tanto dicen mucho de cuál

de este gobierno efectivamente nos preocupan muchas cosas de la política cultural pero también esta y también estas

sectaria puede trasladarse a otras decisiones

y nosotros vamos a estar muy vigilantes en nuestra opinión son decisiones

inaceptables que solo los más talibanes del lugar es decir los representantes de eh bildu comparte esto lo dice todo el único apoyo que usted recibió en la comparecencia de esta misma semana la recibió del grupo eh bildu

los que apoyan las primeras decisiones en relación a la política

de su gobierno y esto ya digo que dice y dice mucho y no dice nada bueno sino todo lo contrario

a los grupos culturales que trabajan en castellano y premiando a los de su cuerda es decir a sus amigos volviendo al sectarismo histórico del nacionalismo la cultura es la que debe defenderse e impulsarse bien sea en euskera o en castellano no hay que discriminar positivamente nada

pero en fin es la historia nacionalista de siempre que piensa que todo lo que se haga en euskera merece apoyo y financiación

medios de comunicación etcétera y todo lo que se haga en castellano es sospechoso todo lo que no sea nacionalista es sospechoso todo lo que no sea nacionalista

al cuello ustedes les tienden la mano al cuello de estas asociaciones a usted se le escapó la siguiente frase en comisión

pero si lo dice es porque lo piensa y así está actuando defenderemos nuestra cultura

el resumen nacionalista de toda la vida nosotros y ellos nuestra cultura y lo que no es nuestra cultura nuestra cultura es decir la nacionalista a la otra cultura a usted se le escapó esa frase pero que resumen perfectamente bien la trayectoria del mundo

nos preocupa esta frase lo dice todo lo explica todo

supuestamente el viceconsejero llegó a decir no sé si en público o en privado dijo estar preocupado por los ataques a la cultura vasca desde la cultura española dijo esto el consejero o no lo dijo

cree que pudo decirlo comparte esta afirmación cuál es la cultura vasca y cuál es la cultura española

es únicamente la cultura que se hace en euskera la cultura vasca es únicamente la cultura nacionalista la cultura vasca es únicamente la cultura desarrollada por sus amigos esto obviamente necesita una aclaración

moción para tratar de corregir estos desvaríos y ahí tendremos ocasión de observar la posición del grupo

y seguiremos en todo caso vigilantes porque este asunto nos importa y nos importa mucho gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

egin beharrekoa y no hay otra interpretación que valga usted podrá hablar

esa es la que usted le quiere buscar no es la nuestra no es la nuestra es la que usted le busca

se las pregunta a él mismo así de claro pero desde luego en el caso de que si dijo me refiero cuando hablamos de la cultura como le he dicho antes sin menosprecio

orden asunto bat uste dugu

gracias otro asunto señora consejera a nosotros nos parece un escándalo que se permita durante días una concentración que trata de impedir

que parlamentarios de eh bildu protejan a una colaboradora de eta no nos extraña pero nos parece un escándalo nos parece un escándalo que la consejera de seguridad

quien fue a ondarroa a apoyar a una colaboradora de eta esto nos parece un escándalo y nos parece un escándalo y un esperpento que la consejera de seguridad

quien fue a ondarroa a intentar que no se detuviera a una delincuente condenada por colaborar

pero es que también efectivamente nos parece un escándalo la cobertura informativa de tales hechos por parte de e i te be y por eso le pregunto para que si puede nos explique la cobertura ciertamente extraña que desplegó e i te be

sobre los hechos acontecidos en ondarroa que no fueron en absoluto un acto pacífico sino que fue un acto que intentó

una colaboradora de eta esta es la pregunta por lo tanto que le hago en referencia a e i te be eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

y como bien sabe la titularidad pertenece al departamento que dirijo pero la gestión de la información e i te be dispone de una autonomía absoluta

para el tratamiento de la información están bien definidos por la propia ley de creación del ente no voy a mencionarlos todos pero voy a citar uno de ellos que además menciona usted en su pregunta la objetividad veracidad e imparcialidad de la informaciones

supone exigir del periodista la comprobación de los acontecimientos que se van a dar a conocer y el contraste por distintas fuentes por otra parte imparcialidad

no se adhieren en la exposición descripción o narración de los hechos me consta que e i te be aplica estos criterios y otros más en la elaboración de la información

veamos cuales son los criterios criterio de actualidad dispositivo de cuatrocientos

criterio informativo cientos devecinos congregados al lado de la condenada criterio de contexto nuevos modos de movilización auspiciados desde la izquierda abertzale entrevistados en etb la mañana de la detención

la consejera de seguridad el lehendakari y representantes de todos los partidos políticos la radio ofrece también una cobertura plural

se subrayó la condena firme por colaboración con banda armada de la detenida y en ningún momento se le trató como una ciudadana modelo

sí gracias señora consejera le pregunto efectivamente le he hecho de la pregunta

del área y como consejera de cultura también lo cierto es que la directora de e i te be compareció para explicar la cobertura informativa

pero no para explicar la cobertura informativa de lo ocurrido en ondarroa y ya sabemos para qué utilizaron los miembros y representantes de eh bildu

para presionar a e i te be de tal modo que en futuras ocasiones el tratamiento informativo fuera el que a ellos más

acudió a esa comparecencia para presionar a e i te be y esto no es una actitud nueva esto es lo que ha hecho siempre en toda la historia el grupo parlamentario de eh bildu y servicios auxiliares en nuestra opinión informativa realizada no se corresponde con los criterios de objetividad e imparcialidad que debe presidir el ente público todo lo contrario pasaron por alto el hecho de que la detención se producía por requerimiento judicial de una sentencia firme por colaboración con organización terrorista no lo resaltaron suficientemente porque esto es un hecho absolutamente fundamental e importante

sin más explicaciones y se dio repetidamente voz a la portavoz de eh bildu en este parlamento

etcétera en ocasiones dio la sensación de que laura mintegi era la enviada especial de e i te be al lugar de los hechos

conexión prácticamente en directo para que ella nos narrara qué estaba ocurriendo

ocurre este tipo de cuestiones y efectivamente daba la sensación

más que condenada por colaborar con eta era una especie de ciudadana modelo cuyos derechos

laminados esta es la historia y esto es lo que hemos visto y e i te be tiene una labor fundamental que realizar objetiva y ser veraz y para defender el estado de derecho y la transmisión de valores éticos y democráticos esta es también la función que debe realizar e i te be y contar los hechos como son y defender siempre
el estado de derecho y es lo que no hizo en esta ocasión eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

señora presidenta buenos días a todos quiero comenzar señalando que la lacra de la violencia contra las mujeres no cesa ayer mismo en esta cámara

primera víctima mortal en euskadi en el dos mil trece y hoy mismo también conocíamos que en santander se produjo otra como ayer pusimos de manifiesto en dicha declaración institucional todas las instituciones públicas los agentes sociales y la ciudadanía debe comprometerse con la igualdad entre hombres y mujeres es necesario

que no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra ninguna mujer tenemos que conseguir

y tenemos mucho trabajo por hacer porque lamentablemente los casos van en aumento

nosotros estamos de acuerdo con ello en el caso del gobierno vasco la participación de varios departamentos desde este grupo queremos destacar en primer lugar que

en comparecencia en esta misma cámara se quiere dar ahora más importancia a la prevención y nosotros estamos de acuerdo que la importancia de la prevención es clara

básica es imprescindible que los poderes públicos actúen de manera preventiva

todo tipo de comportamientos violentos contra las mujeres y esa prevención indudablemente comienza con la educación es preocupante que algunos estudios realizados entre los jóvenes ven determinados comportamientos machista como admisibles y por ello

por la necesidad de instaurar la igualdad entre hombres y mujeres como un principio básico esa es la mejor política preventiva además de la educación también estamos de acuerdo

pero desde luego esta prevención siendo importante y necesaria siendo fundamental no debe dejar de lado la protección y tenemos que intentar a través de la prevención y de la protección que lo que sucedió ayer no suceda nunca más pero lo cierto es que las acciones de violencia de género como le decía al principio lejos de disminuir aumentan según datos dados por usted mismo señora consejera a veintinueve de abril de dos mil trece existen cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho expedientes de mujeres víctimas de género no sabemos si lo que aumentan son los casos o aumentan las denuncias pero en cualquier caso ello implica que las víctimas deben ser protegidas de una forma eficaz

y aunque como decía nosotros estamos de acuerdo en que la respuesta a esta violencia debe ser transversal

lo cierto es que también consideramos que es importante que exista una dirección global conjunta de todas las políticas que las coordine todas por ello nuestro grupo

porque de esta forma se podía profundizar en la atención y en la protección

parte de sus funciones habían ido a parar a emakunde esperemos que funcione pero evidentemente la actuación aunque haya aparecido esa dirección la actuación del departamento de interior antes ahora de seguridad continúan en esas labores de atención prevención y protección de las víctimas

están tramitados por setenta y cuatro personas distribuidas en las veinticinco comisarías de euskadi dedicadas a labores de información concienciación y protección a las víctimas

y dependiendo de que este sea calificado como básico alto o especial las medidas de protección que se le dan son diferentes cuando esta

es cierto que teníamos más dudas de las que tenemos ahora sobre cómo iban a ser

algunas de estas medidas en aquel momento parecía que iban a desaparecer como que iba a desaparecer las escoltas

no van a desaparecer sin embargo no sucede lo mismo con

un protocolo de protección mediante contravigilancias llevadas a cabo por agente no uniformados con coches sin distintivo policiales

y al igual que con la dirección específica de atención a las víctimas de violencia esta unidad específica va a desaparecer como le decía nosotros presentamos la interpelación el quince de marzo y este asunto ha sido profusamente

en el que tanto usted señora consejera como la directora de emakunde explicaron

es porque las razones a pesar de haber leído pormenorizadamente dicha comisión las razones dadas para la eliminación de la unidad mencionada no nos convencieron como decía en febrero y en abril de este año usted presenta su modelo policial un modelo de policía cercana de proximidad

una policía con más presencia uniformada en las calles y volcada en la seguridad ciudadana por ello anuncia que con el fin de dotar de más agentes a la unidad de seguridad ciudadana en concreto prevé que se aumente unos cuatrocientos cincuenta se suprimen distintas unidades

usted es verdad que ha querido desligar esta reestructuración de la separación de la unidad de acompañamiento y supongo que hoy aquí también

pero lo cierto es que fue cuando explicó el aumento de los agentes de seguridad ciudadana cuando usted a la supresión de otras unidades y concretamente también a esta y usted no puso de manifiesto lo que después ha dicho

usted primero se pronunció sobre el modelo de policía que debía de responder al nuevo tiempo sobre la necesidad de tener más agentes patrullando en las calles

los agentes no salen de la nada y los agentes tienen que quitarse de otras unidades y una de las unidades de las que va a quitar los agentes para dotarlos a seguridad ciudadana es esta una unidad

que como le decía llevan a cabo labores de contravigilancia para garantizar la seguridad a mujeres víctimas de malos tratos y que han detenido a treinta presuntos maltratadores usted señora consejera ha puesto de manifiesto que no había especialización en la labor realizada por estos agentes opinión que contrasta con la manifestada por los propios agentes que componen esta unidad y por las propias asociaciones de mujeres de víctimas de malos tratos estas últimas estaban

y ponen algunas de ellas en duda que la efectividad de la fórmula propuesta ahora por el parlamento vaya a ser mayor que la que existe en este momento existía una interrelación que ahora va a perderse además usted puso de manifiesto en esa comparecencia que se trataba de una unidad

de la unidad de violencia de género pero suponemos que aunque separada estaría estrechamente coordinada es cierto se lo decía que después de hablar de reestructuración

que de esta manera la protección a la víctima se va a hacer de una forma más cercana con un mayor

los agentes de la unidad de acompañamiento a juicio de este grupo esta decisión va a mermar la calidad del servicio de protección ofrecido a las víctimas no compartimos que cuando en muchas materias se tiende a la especialización ahora se produzca una diversificación del servicio y ello creemos no va a implicar sino todo lo contrario mejor funcionamiento la gestión usted lo ha dicho la va a realizar el grupo de violencia de género de cada comisaría pero la contravigilancia la van a realizar los agentes de la misma pero nosotros nos preguntamos cómo se va a hacer cada semana y cada turno van a ser distintos los agentes que se va a destinar a esta labor quién un día va uniformado al día siguiente va a ir sin uniforme

cuántos agentes los van a tener cree que los agentes de la unidad de contravigilancia no tenían suficiente

y además cree usted que el conocimiento geográfico es lo más importante no será más importante tener conocimiento de quién puede ser el presunto agresor

es necesario que estas rutinas las conozcan una multitud de agentes y cuando se traslada a otro municipio

nosotros creemos como le decía que precisamente

en esas unificaciones que se van a hacer o que se pretenden hacer por ejemplo unificar las ertzain etxeas de basauri y de galdakao cómo se va a hacer más

se va a tener que conocer por parte de los agentes nosotros creemos que

a estas cuestiones porque no acabamos de ver que la eficacia vaya a aumentar como le decía sino todo lo contrario

antes de pasar a responder a su interpelación también yo quiero expresar desde aquí mi apoyo y solidaridad con la familia

asesinada ayer en laudio una nueva víctima de la violencia de género

en euskadi una víctima que se suma a la larga lista de víctimas a la que hoy se ha incrementado otra persona una mujer de treinta años asesinada en santander por su expareja y también quiero añadir la agresión

sufrió una trabajadora social en bilbao una vez más estas muertes y estas agresiones nos sitúan ante el espejo de esta cruda y trágica realidad mujeres que pierden su anonimato víctimas de esta barbarie

y desde aquí quiero hacer este llamamiento que nadie calle por nada

de las mujeres que sufren estos malos tratos se llame violencia de género

es de vital importancia denunciar ya no lo dejes para luego debería ser el lema que todas las víctimas de este sufrimiento

y no solamente las víctimas sino también el entorno no lo dejemos para luego ertzain etxeas oficinas municipales policía local servicios sociales asociaciones de ayuda son muchas las puertas que podemos tocar y abrir acudir y denunciar es importante que lo hagamos ya sin dejarlo para luego ya lo dije en la comisión de instituciones seguridad y justicia y le vuelvo a repetir en este pleno

respecto a los servicios que nos corresponde ofrecer desde el departamento de seguridad toda la mujer que necesite algún tipo de protección sea víctima de violencia doméstica o víctima de violencia de género la ha tenido y la va a seguir teniendo y por responsabilidad creo que nadie debe sembrar dudas

sobre estas cuestiones porque la lucha contra la violencia de género es un servicio policial y una labor social que forma parte de los valores nucleares

de las políticas de seguridad que estamos desarrollando y forma parte por tanto de los valores que imbrican

y así va a seguir siendo y cómo ya lo dije trabajando en la atención la prevención y la protección a aquellas víctimas de malos tratos cuyos expedientes

en cada una o en alguna de las veinticinco comisarías en los servicios de atención

en nuestras comisarías hay setenta y cuatro profesionales son los encargados de tramitar y gestionar los expedientes uno por cada unidad y asignar uno o una ertzaina de referencia que ejerce el contacto directo que tiene esa relación con la víctima que le ofrece un trato próximo personalizado que realiza las entrevistas periódicas según necesidades y riesgos y siempre y en cualquier caso con una periodicidad mínima de dos meses

y digo según necesidades y riesgos porque la ertzaintza desde el momento en que tiene conocimiento del caso hace una valoración del riesgo basándose en el cuestionario que ya comenté

elaborado en colaboración con el departamento de psicología clínica de la universidad

en su intervención señora llanos usted ha referido aquí la desaparición la posible desaparición de la unidad de acompañamiento y da por supuesto que la supresión de esta unidad va a llevar aparejado en la eliminación del servicio que venían prestando o al menos minorando

esta es una de las alarmas que por responsabilidad no deberíamos contribuir a propagar y en esto quiero ser muy clara con unidad de acompañamiento

va a seguir prestándose con todas las garantías alcanzadas hasta ahora sin restar ningún recurso a ninguna de las mujeres que están sufriendo

servicio de protección una cosa es que la afronte cambios organizativos en la mejora estructural de los servicios que ofrece y otra cosa bien distinta es que se vayan a eliminar servicios y en esto voy a ser tajante toda la persona que solicite que demande

algún nivel de riesgo recibirá y seguirá recibiendo los mismos niveles de protección que hasta ahora este es el compromiso que ha adquirido el departamento y

ytambién me gustaría recordar que la llamada unidad de acompañamiento

sí bien a raíz del cese de la violencia de eta en dos mil once y minorada la necesidad de estos servicios de esta unidad es cuando

destina a prestar el servicio de contravigilancia a las mujeres amenazadas mujeres víctimas de violencia de género violencia doméstica

y que en determinadas horas del día vigilan a la mujer asignada para protegerla una labor de protección que cuando deje de existir la unidad de acompañamiento va a seguir siendo prestada

gestionada desde la comisaría de referencia con personal de la propia comisaría

ahora en cuanto con personal de la propia comisaría las labores preventivas labores preventivas seguimiento de hábitos de rutinas que se hace con personal

vehículos con distintivo usted señora llanos me pregunta por la protección a víctimas

a demás de las treinta mujeres a las que se está prestando este servicio de contra vigilancia con personal no uniformado por parte de la unidad de acompañamientos hay otras cincuenta y tres personas víctimas que llevan vigilancia permanente de escolta vigilancia veinticuatro horas y desgraciadamente

tienen activadas las tareas preventivas a las que hacía referencia hace un minuto seiscientos cuarenta y tres sobre rutinas y mil seiscientos veintinueve sobre zonas de protección tareas preventivas que como le decía la realizan ertzainas de las distintas comisarías que efectúan estas tareas con

que aunque son medidas obligatorias exclusivamente para las víctimas que tienen nivel de riesgo especial

a aquellas personas que tienen un nivel de riesgo alto o básico y se seguirá prestando

y veintinueve mujeres disponen de una pulsera electrónica

a otras muchas mujeres se les presta protección y acompañamiento a juzgado en su primera comparecencia y a otras muchas se les da la información y el asesoramiento que precisan en total

a las que se les da algún servicio de atención prevención y protección que vuelvo a repetir el departamento de seguridad va a seguir ofreciendo ofreciendo

desde la comisaría de referencia y por qué desde esa comisaría de referencia

porque es la que va a tener el único y directo contacto con las víctimas una medida que no solamente ha sido aplaudida por las asociaciones

de las mujeres que son víctimas de violencia de género sino también por el propio servicio técnico del gobierno vasco que estaba adscrito a la dirección de víctimas de violencia de género por tanto este tipo de

de alarmas como digo infundadas creo que está generando mucho daño y creo que son temas suficientemente sensibles para andar con muchísimo cuidado y para no despertar alarmas ni sospechas infundadas

de las personas que en este momento están sufriendo o que en un futuro pueden sufrir este tipo de violencia por tanto reitero vale

con la prestación de los servicios le garantizo que la prestación de los servicios va a continuar ofreciéndose con la misma

o mejor calidad que lo que se ha hecho hasta ahora muchas gracias

gracias de nuevo señora presidenta señora consejera a una le sorprende que cuando

por un servicio prestado de una determinada forma y que se va a cambiar se pretenda que los grupos políticos

porque entonces generamos alarma y no sé ha dicho usted que no iba a admitir o que no eran admisibles determinados comportamientos porque eran generadores de alarmas yo no sé si los comportamientos a los que se refiere

y cuestionando si la organización de un servicio es mejor o no es mejor

yo creo que en todo caso la alarma estará producida con sus respuestas si su respuesta es lo suficientemente clara como para que las mujeres víctimas de malos tratos tengan claro que el servicio va a mejorar

si no lo tienen tan claro es cuando se producirá la alarma pero la alarma señora consejera no está en la pregunta

yo ya le he dicho nosotros cuando planteamos la interpelación la planteamos sobre toda la protección sobre todas las medidas de protección porque parecía que iban a sufrir algunas de ellas muchas modificaciones en algunas usted ha ido clarificando cual va a ser la actuación del departamento pero en concreto en esta no

la interpelación usted dice que claro que se va a mantener no lo dudo y que nadie que vaya a pedir la protección no la va a tener no lo dudo pero no solamente se trata de dar protección se trata de dar la mejor protección posible y esa es la cuestión señora consejera la mejor protección en este caso

o la mejor protección era como se estaba realizando hasta ahora porque mire es verdad que cuando surge esta unidad de acompañamiento no surge

las mujeres maltratadas no llevaban escolta y después

era un servicio bueno y usted dice que es que la gestión la estaba realizando la comisaría y también antes

y ahora es la propia comisaría y no me ha contestado siguen sin contestarme a las cuestiones que yo le he planteado y es cuántos agentes van a tener conocimiento de la rutinas

porque si son los agentes propios de la comisaría hay tres turnos que van rotando y que además cuando se van haciendo nuevas modificaciones

va a ser más amplio porque se van a unificar las patrullas de la seguridad ciudadana no ha contestado a si va suponer un mejor usted nos señala que sí que va a ser así el camino se demuestra andando pero yo creo que en este tema si algo

se podía haber planteado el redimensionamiento de la unidad se podía haber planteado otro tipo de cuestiones pero no eliminar la unidad sin más tampoco eso se lo dejo para esta pregunta porque se le preguntó en la comisión y no contestó

por una parte decían que los miembros de esta unidad no tenían formación pero luego por otra parte señaló en esa comisión que

o no se va a producir y yo una última cuestión usted ha dicho que parece que va a desaparecer no sé si tiene ya claro que va a desaparecer la unidad o no pero en cualquier caso como usted ha dicho que

es un documento vivo un documento abierto a posibles cambios y aportaciones usted está dispuesta a que si se comprueba que la eficacia de la protección en las comisarías

va a replantearse volver a incluir esta unidad en dicho documento nada más muchas gracias

eskerrik asko señora llanos no sé si lo que le preocupa es el servicio de protección a las mujeres desde su intervención

le preocupa el mantenimiento de la unidad de acompañamientos no sé cuál es su preocupación última o le preocupa cómo se va a unificar si es que se va a unificar galdakao y basauri cuestión que yo nunca la he planteado aquí

no sé exactamente qué es lo que le preocupa porque creo que ha mezclado

preocupación primera y preocupación última efectivamente preguntar no despierta alarma pero alarma

como lo han hecho determinados grupos políticos se trata de dar la mejor protección coincido con usted

de protección por eso este cambio que como le digo aplaudido por los propios agentes que están trabajando en materia de violencia doméstica violencia de género y también aplaudido por las asociaciones que trabajan en favor de estas mujeres

la protección a las víctimas de violencia de género ha sido es y va a seguir siendo la necesaria para garantizar la mejor seguridad nuestro modelo como le decía

se haga de todo el conjunto se haga desde las propias comisarías porque me dice usted cuántos agentes van a conocer

cuántos agentes las conocen ahora ahora las mujeres tienen que contar sus rutinas dos veces en la propia comisaría a los agentes que hacen la contra vigilancia para que puedan determinar y planificar las actuaciones ese doble relato se va a evitar de

es decir de esta manera evitamos esa doble victimización cuántos agentes van a conocer los necesarios para prestar ese servicio lo mismo que ahora

cuántos agentes conocen las rutinas para llevar las labores de vigilancia preventiva cuántos agentes conocen las rutinas para hacer la labor de contra vigilancia los necesarios para mantener los turnos igual que ahora luego desde esa perspectiva no va a existir ningún cambio el único cambio

para simplificar como le he dicho el relato que tienen que hacer las mujeres para simplificar y dar una mejor protección para ser más eficaces en la utilización de los recursos por tanto

por supuesto que hay una parte importante en ese plan estratégico que es la parte de evaluación evaluación para corregir cuando haya que corregir y mejorar en todo lo que podamos

gracias señora presidenta bien como ya le han dicho aquí señora consejera el miércoles quince de mayo después de seis días poniendo en jaque al estado de derecho fue detenida en ondarroa

a cámara lenta señora consejera motivada por su indecisión y por lo que parece ser un miedo

y no es la primera vez señora consejera que se arruga ante los desafíos del entorno radical una escena similar

el diecinueve de abril se detenía a seis miembros de segi condenados por pertenencia a banda armada después de permanecer acampados desde el nueve de abril

señora consejera y no se me vaya a alterar pero cuando estaba redactando la pregunta para este pleno esta parlamentaria se cuestionaba a quién hacerla

porque nuestra intención era preguntarle por el operativo pero parece que la dirección del operativo o al menos esa fue la imagen que se dio era compartida vía telefónica entre usted

ella tenía que calmar a los congregados y usted debía por orden suya actuar de una manera ordenada y sin violencia y esto nos parece muy preocupante señora consejera este es el nuevo tiempo este es su nuevo modelo policial

judiciales lo que hace es plantearse cuándo cumplirlas tardar cinco días en ejecutarlo

informar a quien ha sido parte activa de la oposición a la detención del cómo y del cuándo se va a producir la misma en qué país serio

una policía que va a ceder ante las exigencias de la izquierda abertzale para que no pueda ser acusada por estos de enfrentarse a su pueblo hace días debatíamos en esta cámara la reorganización de la ertzaintza

para esto era la reorganización para destinar trescientos agentes antidisturbios veinte furgonetas

y tardar seis días en efectuar una detención que se podía haber saldado en un tiempo

dispositivo muy inferior y por qué no se practicaron más detenciones identificaciones y puestas a disposición de la autoridad judicial a pesar de que hubo actos delictivos de resistencia activa y desacato a la autoridad esta

de actuar esta va a ser la forma de contestar a la estrategia de bildu de entorpecer la labor de la justicia porque los muros contra el estado de derecho parece que van a seguir

señora consejera va a permitir otro muro de la vergüenza como fue ese otro muro de impunidad nada más

eskerrik asko presidente andrea señora llanos me remito a la respuesta que he dado ya en dos ocasiones en este pleno en este parlamento

mire señora consejera no sé si calificarlo como falta de respeto

pero yo creo que cuando una parlamentaria hace una pregunta por lo menos merece contestación lo que pasa es que a lo mejor no la tiene porque como decía usted

ha abordado estas detenciones con una timidez que raya la complicidad y aquí

la suya un clamoroso suspenso los agentes a sus órdenes

no llegó ni aun mísero cinco y esto nos recuerda a otras épocas señora consejera a otras épocas

se nos amedrentaba se nos amenazaba y la ertzaintza tenía orden de permanecer dentro de las furgonetas para no molestar a la izquierda usted que defiende una policía cercana y eficaz una policía integral no puede permitir estos desafíos de la izquierda no puede defender una policía de escaparate cuyo objetivo sea no molestar a bildu porque de esa manera no está sino contribuyendo

porque si hemos llegado hasta aquí no es por hacer concesiones a eta sino por defender el estado de derecho

haciendo reverencias policiales a este mundo y desde luego

señora llanos la respuesta es obvia la ertzaintza

son criterios policiales en lo estrictamente policial y con criterios policiales y judiciales

y eso es exactamente lo que se hizo lo que hizo recientemente tanto

por tanto seguiremos desempeñando las funciones que nos corresponden en el cumplimiento de órdenes judiciales bien sean detenciones o de cualquier otro tipo de actuaciones policiales que se requieran desde el poder judicial

integral que lo es una policía que viene regulada por la ley propia ajustada las funciones de

asignadas sin que hayamos desalojado a más de doscientos personas

y trasladado ante el juez que hayamos aplicado las diligencias administrativas por incumplimiento de ley de seguridad ciudadana a diez personas que hayamos

a prisión de más de diez personas en poco más de un mes usted cree que no es una medida y tareas realizadas

son tareas policiales que se planifican como le digo se trabajan y desempeñan con criterios de investigación y de profesionalidad policial

por tanto ni usted ni nadie es quien tiene que decir cuándo cómo y de qué manera se hacen es el criterio estrictamente policial quien lo determina

eso es lo que se reclama y se espera de la ertzaintza y se le reclama como policía propia

y en los casos de donostia y ondarroa hemos resuelto estas situaciones con absoluta

con proporcionalidad y profesionalidad por eso sin ningún tipo de exceso

a las actuaciones de la policía y ese respeto también a las decisiones y a las adoptadas por esta consejera cosa a la que usted ha faltado en su intervención eskerrik asko

que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre la persona

o parlamentario o el decoro y la dignidad de un grupo parlamentario

o al representante del grupo aludido el uso de la palabra por tiempo no superior a cinco minutos para que sin entrar en el fondo del asunto en debate

se han hecho juicios de valor se ha hablado de cuál era mi motivación de cuál era mi objetivo de cuál era mi actitud
se ha llegado a decir que mi motivación era mintegi andreak zehaztasunak zehaztu

no voy a insistir hay medios para hablar cuando no se puede expresar hori ez da alusioaren parte mintegi andrea no puedo expresar todas las alusiones que se han hecho hoy aquí juicios de valor

en esta casa y lo siento de verdad lo siento mucho porque precisamente
iba a corroborar parte de lo que ha dicho la consejera e iba a aclarar una serie de ez da hori zure momentua mintegi andrea que creo que son necesarias

constatar el precedente el grave precedente que se acaba de establecer en esta cámara porque a lo largo y ancho de todos los plenos

el triste espectáculo que acabamos de semper jauna ez daukazu hitza gai zerrendako

creo que tanto usted como yo compartiremos con las personas que dedican su profesión en el ámbito

mejorar en la gestión de las emergencias y creo también que compartiremos que un modo para lograr ese objetivo una herramienta clave para lograr ese objetivo es una formación homologada que puedan recibir todas las personas con una dedicación actual

estamos hablando de una materia de carácter multidisciplinar que requiere de la intervención de muchos factores y sobre todo

eficaz de todos ellos consciente de esa situación y necesidad la anterior dirección de la academia vasca de policía y emergencias de arkaute impulsó una iniciativa pionera llegó a un acuerdo con la universidad pública vasca para que de manera consorciada se programaran desarrollaran

que dieran lugar a la obtención de un título propio de grado en gestión de seguridad y emergencias el trabajo conjunto realizado entre la academia de arkaute y la upv

que garantizan los estudios de tres años de duración para dos promociones de profesionales estos estudios como usted bien sabe

la iniciativa se ha convertido en un referente en el ámbito de la seguridad y las emergencias pues aparte de su carácter pionero

que unidos garantizan la calidad de la formación y el éxito en la consecución de los objetivos programados pero además contamos con una aceptación amplísima por parte del sector

con ochenta participantes quedando la convocatoria de dos mil doce ciento sesenta aspirantes en lista de espera

a pesar de estos antecedentes hemos tenido conocimiento que a mediados del mes de marzo se ha comunicado a la upv por parte

la intención de no suscribir un nuevo convenio de colaboración lo que pone en peligro la continuidad de la oferta del título de grado como puede usted imaginarse esta noticia ha creado una gran incertidumbre y desilusión entre los docentes y aspirantes

y también en el conjunto del sector de emergencias y seguridad le puedo asegurar señora consejera que también a nosotros los socialistas vascos nos genera una gran preocupación que se puedan tirar por la borda tantas expectativas y tanto trabajo realizado en la buena dirección

a la siguiente pregunta cuál es el criterio del gobierno vasco en relación a su contribución

eskerrik asko como usted ha explicado señor unzalu y como usted ha explicado en la exposición de motivos

la academia vasca de policía y emergencias propuso a la universidad del país vasco la puesta en marcha de un título propio de graduado en gestión de seguridad y emergencias se trata de un

propio de tres años a razón de sesenta créditos por año como usted bien conoce por tanto

oficial universitario sino que es un título propio sirve para obtener como usted decía el graduado en gestión de seguridad y de emergencias y se imparte

el primer convenio de la promoción dos mil once dos mil catorce se firmó el siete de octubre de dos mil once por un importe de doscientos once mil euros y el segundo el

periodo dos mil doce dos mil quince este departamento va a cumplir y va a cumplir escrupulosamente con los compromisos adquiridos tanto

como a la gestión en todos los aspectos que recogen en estos convenios pero efectivamente el departamento no ha previsto establecer el ampliar este convenio a años futuros y por qué porque los valores formativos y académicos que se dan en este curso se pueden impartir perfectamente
a través de la propia academia de arkaute eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea unzalu jauna zurea da hitza

las notas porque ha repetido lo que yo le he dicho con otro formato pero al final para decirme lo que ya sabíamos

porque usted no me ha contestado lo único que dice es que se puede hacer desde arkaute pero yo

en la colaboración y complementariedad entre dos instituciones la upv y la academia de arkaute que es lo que le da al grado precisamente un tratamiento específico

de grado no propio no es un título

no me ha planteado si es un problema económico o no porque también de eso se puede hablar lo que usted no ha contestado

continúan o sea dice que se puede hacer desde arkaute pero usted no ha hecho aquí un planteamiento de

poner eso en arkaute qué profesiones van a poder estar allí no

insistirle que como ya he concluido en la primera parte de mi respuesta la academia vasca de policía

convenio de colaboración para la puesta en marcha de lo que sería una tercera promoción del título propio de la universidad del país vasco de graduado en seguridad y emergencias

ni los valores como le he dicho antes formativos y académicos del curso de graduado de seguridad de emergencias

subvencione con recursos especiales unos estudios académicos

en el ámbito formativo de la propia academia lo cual no quita para que pueda haber colaboraciones con

formativos este título como usted bien sabe va dirigido a profesionales del área que desean ampliar o sistematizar conocimientos en el ámbito de la seguridad de la gestión de emergencias y en la prevención un área dónde

de seguridad y emergencias por tanto un área muy limitado y que

con estas treinta y cuatro personas que están en esta primera promoción y las treinta y nueve que van para la segunda promoción consideramos que de momento está suficientemente cubierto por tanto incertidumbre y falsas expectativas despertaría si

ubera andrea efectivamente como usted ha dicho

a petición de la dirección del hospital de basurto y con el consentimiento de este consejero procedió a desalojar a un grupo de personas que habían decidido ocupar y mantener

como seguro que usted conoce el encierro había sido pertinentemente anunciado en los medios de comunicación los días previos se supone

con la intención de ayudar a los ciudadanos que iban a ser atendidos

y en el resto del hospital como usted ha relatado desde primera hora de la mañana se instalaron en mitad

una tienda de campaña que no sé si usted la vio yo le voy a dejar aquí una foto luego para que la vea encima de la mesa

sí entorpecía la entrada al hospital a las consultas

desde ese momento hasta las doce del mediodía la dirección del hospital

con el comité de empresa en más de una ocasión el cese de esta actividad sin éxito alguno

hasta el día siguiente alrededor de las doce del mediodía las personas

alrededor del cual están ubicadas todas las consultas del hospital de basurto comenzaron a gritar consignas y a alterar el adecuado funcionamiento del centro asistencial y aún así la dirección del hospital

a retirar la tienda de campaña y mantener el orden preciso para que los pacientes

y los trabajadores señora ubera en el hospital de basurto trabajan tres mil y pico personas como usted dispone de las fotos cuente

sí eran trabajadores del centro o eran liberados sindicales que se lo aclararé convenientemente

y los trabajadores pudieran desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas

habría que valorar si los trabajadores estaban en las consultas prestando el servicio o en el hall las personas concentradas

y colocando en su lugar varias camillas camillas del hospital cuya finalidad es dar servicio a los pacientes y que en ningún caso tiene la finalidad de convertirse

ni en mesas para hacer un hamaiketako que es lo que ocurrió a continuación la dirección del centro les pidió retirar las camillas y ante la negativa y la alteración del normal funcionamiento del hospital

o mejor dicho en este caso de los encamillados durante el desalojo

como prueba la ausencia de personas lesionadas dicho esto quisiera señalar públicamente que

con el consentimiento del departamento de salud la gerencia del hospital

tres horas de alteración de la rutina y del normal funcionamiento del centro segundo siempre que consideremos que se está vulnerando la dignidad de los pacientes de los familiares y de los trabajadores que no desean sumarse a las protestas si no hay posibilidades de una negociación civilizada muy a nuestro pesar volveremos a solicitar la intervención de la ertzaintza

mientras sea nuestra responsabilidad no permitiremos que ningún paciente ni ningún familiar tenga que soportar un encierro una acampada

en definitiva la utilización del sistema sanitario público que nosotros sí defendemos para intereses laborales que pudiendo ser legítimos

las mesas sectoriales estaban convocadas la negociación colectiva en el sistema sanitario no se debe contraponer a la dignidad de las personas

por falta de salud o por la necesidad de asistencia sanitaria no lo consentiremos es nuestra obligación y no vamos a renunciar a ella osakidetzan

este es el trato que a su juicio merecen los ciudadanos vascos que confían a diario en osakidetza es esta la manera que usted entiende que es

y haremos lo que esté en nuestra mano para evitarlo estamos seguros

y de hecho le repito trabajan en el hospital tres mil y pico trabajadores opinan lo mismo

y a la discrepancia laboral y su deber de respetar y atender adecuadamente a los pacientes para finalizar quiero dejarle claro que las personas que pretendían encerrarse en su mayoría

que saben sobradamente que respetamos su derecho a manifestarse a quejarse y a hacer huelga

se respete y sé que lo saben sobradamente sobre todo yo que he sido gerente de ese centro

y sé los años que llevan en las tareas de representación sindical que en algunos casos son más que trabajando nosotros vamos a defender el sistema sanitario público

pero no vamos a contraponer derechos laborales y derechos de los ciudadanos arau hauek hausten direnean ez dugu gure zerbitzua kaltetzea

aunque no le agrade coincidimos en la visión que tenemos del sistema sanitario nosotros

universal y de calidad le guste a usted o no

no es muy transparente abrimos trescientos y pico centros cada día dieciséis hospitales los tenemos llenos viene toda la población cada día cada día efectivamente nos preocupan los trabajadores

llevamos con ellos treinta años nosotros con el partido socialista en algún período llevamos con ellos treinta años y no les quepa ninguna duda tenemos voluntad de intentar seguir con ellos treinta años más

son como son hemos bajado el presupuesto del departamento un cuatro coma dos por ciento que en la situación económica actual le costaría a usted poner un ejemplo

donde el gasto sanitario se vaya a mantener como aquí y sino

no estamos recortando lo que usted dice no hemos dejado de hacer sustituciones ni cubrir vacantes no hay una apocalipsis en osakidetza

la actuación de la dirección del hospital de basurto al defender el correcto funcionamiento del centro e intentar solucionar el problema negociando fue la adecuada hoy no hay ninguna excursión de la ertzaintza y sabe por qué no hay ninguna excursión de la ertzaintza

el proceder de la ertzaintza en el hospital de basurto fue totalmente correcto e impecable por lo que quisiera aprovechar la oportunidad par dar las gracias

a sus mandos y a su consejera este departamento no va a permitir que se vulneren en cualquier caso la dignidad de las personas que se atienden

a ser atendidos en las condiciones adecuadas respetamos los derechos laborales de los trabajadores siempre lo hemos hecho

si lo respetamos pero coaccionar a los pacientes hacer acampadas merendar encima de las camillas dentro de una instalación

por el riesgo de incrementar las infecciones hospitalarias porque hablamos de hospitales de pacientes de personas no lo vamos a tolerar la negociación colectiva

pero tiene otros cauces lo hemos dicho por activa y por pasiva el acuerdo de condiciones laborales es para nosotros una prioridad y lo repito una prioridad pero para ponernos de acuerdo necesitamos la voluntad de al menos dos partes alguna de ellas no viene a las reuniones

nada más por nuestra parte pongámonos a ello la mesa sectorial desde nuestra posición está abierta nos encantaría tener un acuerdo de condiciones laborales

el pasado siete de febrero varios medios de comunicación como usted sabe reflejaron

en las que sorprendentemente anunció un nuevo retraso en la ejecución en la puesta en marcha

del tren de alta velocidad en euskadi la conocida y vasca la verdad es que a lo largo de su última legislaturas sucesivos conejeros de este gobierno

diversas fechas alguna a modo de bingo tocará empezamos con el año dos mil trece

continuamos con el año dos mil dieciséis su predecesor y hoy usted

y las razones por estos continuos retrasos en la puesta en marcha de la y vasca gracias señora consejera eskerrik asko semper jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria oregi anderea zurea da hitza

dice usted y así lo decía también en el texto que me envió sorprendentemente usted anunció nuevos retrasos

ni son nuevos retrasos lo único usted me pregunta en base a qué criterios anuncié yo estos nuevos retrasos

me remito a los papeles y a los documentos que tenemos encima de la mesa a los proyectos y a las obras que están en marcha y lo único que hice fue decir leer

ni traer ninguna sorpresa encima de la mesa y por supuesto no traer nuevos retrasos las obras que están en marcha y que ejecuta el gobierno vasco son la parte guipuzcoana de la y vasca como usted sabe bien y

terminamos la obra civil del último tramo en el último trimestre del dos mil dieciséis lo he dicho ya no sé cuántas veces por escrito y de manera también oral dos mil dieciséis obra civil a partir de ahí ya hay dos años para hacer la superestructura esto nos pone puedo decirlo o no decirlo pero si lo digo yo o lo dice usted pues dos mil dieciséis más dos años son dos mil dieciocho

que la está ejecutando el ministerio como también sabe usted bien pues tiene varios tramos sin licitar de hecho y el que más nos preocupa es el nudo de mondragón elorrio bergara

los hemos compartido con el ministerio los vemos en las comisiones de seguimiento y lo que sí sabemos es que

tienen cuarenta y dos meses de plazo cuarenta y dos meses de plazo no he sacado la cuenta pero todavía sin licitar y cuarenta y dos meses de plazo

pongo este tema encima de la mesa estamos esperando a ver cuando licitan porque esto

a las tres capitales están sin redactar también hemos pedido al ministerio que pongamos en marcha las comisiones de trabajo para las entradas a las ciudades en la última reunión tenemos el compromiso la última reunión fue recientemente no recuerdo el día exacto con el secretario de estado

a lo largo del mes de junio cosa que espero que cumplan nada más gracias

gracias señora consejera por sus explicaciones muy precisas

para la construcción de la y vasca es alabada

de una encomienda de gestión que el tramo guipuzcoano lo ejecute el gobierno vasco descontándolo luego de él vía cupo parece razonable que si es tan buena esa fórmula de gestión

por lo menos de guante blanco o de colaboración nos sorprende mucho cómo

su departamento se empeña una y otra vez y permítame esta expresión en

al ministerio de fomento con la ejecución con los plazos y con los ritmos

porque no en vano hasta su viceconsejero el señor aiz como usted bien sabe

el mapa de la alta velocidad en toda españa y ha anunciado también retrasos nada más y nada menos que en burgos y hasta donde yo sé ahí las competencias suyas no llegan

lo que nos queda también claro es una cosa y es que los consejeros que a usted le han precedido y de momento yo no voy a dudar de usted

frivolidad o una irresponsabilidad a la hora de establecer fechas no voy a decir que no han dicho la verdad

con poca responsabilidad si la fecha del dos mil dieciocho es por fin la fecha bienvenido sea

es una comparecencia en comisión en donde tengamos la oportunidad de conocer

bien insisto señor semper ni yo ni mi viceconsejero el señor aiz anunciamos

las respuestas del señor aiz el otro día también iban en esa línea lo único que hizo

en las que se le preguntaba después de haber estado después de haber participado en unas jornadas en las que también estaba el ministerio en valencia y en las que se habló de ese tema

y siempre intentaré darle los datos lo más

hemos respondido ya a bastantes preguntas por escrito sobre estos temas siempre hemos trasladado los datos como los tenemos como no puede ser de otra manera

trabajar y ejecutar las obras de la manera más eficiente posible

y eso además de un logro indiscutible del conjunto de la sociedad vasca es sin duda una herencia de nuestros antecesores también un patrimonio de la euskadi actual pero sobre todo un legado a preservar para las generaciones venideras debemos ser capaces pues

en primer lugar desde los poderes públicos que son quiénes tienen el mandato democrático de seguir velando por preservar la sostenibilidad del propio sistema y de sus pilares pero también asumiendo un compromiso individual como ciudadanos y ciudadanas a quienes asiste el derecho a una sanidad pública universal y de calidad y también la obligación de hacer un uso racional de esos recursos además de cuidar responsablemente de su propia salud noski euskal osasun sistemaren profesionalek

ese agradecimiento ciudadano a todas y cada uno de los

en un servicio ejemplar y de referencia dentro y fuera de euskadi tercero mostrar el compromiso inequívoco del parlamento vasco gobierno vasco y del resto de instituciones vascas en general

del sistema vasco de salud y la preservación de su naturaleza pública universal y de calidad eta laugarrena jaurlaritzak